erabat liberalizatuko dira hiri osoan como digo al considerar los hechos que motivan la necesidad de modificar la actual ley de actividad comercial hay que tener en cuenta que el real decreto ley veinte barra dos mil doce especifica que aquellos municipios que no delimiten acotando el espacio y el tiempo de gran afluencia turística automáticamente verán cómo se impone la liberalización durante todo el año y en todo el municipio en una primera fase se incluyeron en esta normativa catorce municipios entre los que se encontraba bilbao

y dos años después se redactó un segundo decreto ley el dieciocho barra dos mil catorce

y en este caso se incluye además donostia san sebastián hay que recordar que el gobierno vasco ha recurrido

este real decreto ley y que además el artículo

establece la competencia del gobierno vasco en materia de comercio interior y su capacidad para diseñar la política comercial que considere oportuna el estado en el ejercicio de sus competencias básicas por tanto no puede agotar la regulación de una materia en este caso la comercial sin margen normativo para el propio estatuto y para euskadi por este motivo como he dicho el gobierno vasco recurrió el treinta de diciembre de dos mil catorce que fuerza a nuestros municipios a aplicar horarios no deseados en el sector comercial vasco y lo hicimos hace casi ya un año estando actualmente a la espera de una resolución además de plantear este recurso el gobierno vasco considera necesarios también ejercer en otros

en el ejercicio de sus competencias el principio de no liberalización total de horarios comerciales en euskadi y además hacerlo en consonancia con el sector

ley de actividad comercial que es la que presentamos en nuestro planteamiento de modificación los ayuntamientos tienen un papel protagonista

de definidores podríamos decir de aquellos entes que van a definir cómo se va a ejecutar el sector participa y da su opinión por la obligatoriedad de abrir un plazo de alegaciones que se establece en esta modificación de esta forma el establecimiento de zonas de gran afluencia turística no genera ninguna obligación de abrir sino que reconoce la libertad

a las empresarias y empresarios que utilizarán la mencionada modificación atendiendo a su política comercial individualmente diseñada ellos tienen la última palabra no planteamos más los establecimientos comerciales para atraer más turismo no es esa la razón actualmente ya tenemos un turismo creciente lo que posibilitamos es que en los dos meses de mayor incidencia de esta afluencia turística en julio y en agosto demos cobertura a más de medio millón de personas

que son nuevos potenciales consumidores y consumidoras según el barómetro del comercio minorista vasco la incidencia del turismo en la actividad comercial

a uno de cada cuatro establecimientos por tanto genera un incremento de gasto comercial

quiero aclarar además algo importante sobre esta modificación hemos trabajado para acotar el alcance de los escenarios propuestos en la normativa que plantea el estado

la modificación que se plantea va a permitir mantener la diversidad de la oferta comercial evitando la completa liberalización de horarios y al mismo tiempo otros aspectos igualmente necesarios para mejorar la competitividad del sector comercial vasco legearen aldaketaren xedapen zatiak

garatzeko estamos obligados a responder a las nuevas necesidades del sector comercial de euskadi que junto con la hostelería aportan

y emplean un trece coma nueve por ciento de la población ocupada vasca es un sector que lucha y que sigue luchando en un entorno cambiante globalizado

y sobre todo con consumidores que realmente a día de hoy tienen hábitos muy distintos a los que tenían hace unos años euskal merkataritza sektorearen negozio zifra

beraiei erantzun behar diegu el sector comercial vasco comienza a apreciar una cierta recuperación aunque debemos ser prudentes como en cualquier otro aspecto porque restablecer los niveles de consumo que teníamos en el año dos mil nueve va a ser realmente complicado

con un moderado optimismo y estamos convencidos que la propuesta de modificación de ley que realizamos y que presentamos hoy ayudará a reforzar esta posición porque responde a necesidades muy claras y muy concretas

estarán mejor atendidas mila esker eskerrik asko

kaixo egun on guztioi hoy vamos a tratar
sobre una propuesta de modificación de la ley de la actividad comercial que tiene un único objetivo crear

puedan abrir en días festivos en determinadas zonas y fechas y luego explicaré por qué el único objetivo es que las grandessuperficies puedan abrir y por qué esta norma afecta expresamente

es un tema delicado y quisiera contextualizar la situación general del comercio y las políticas que se están desarrollando en los últimos años hacia este sector

que quizás no tengala consideración de estratégico que puedan tener otros sectores

en el conjunto de la economía rondando el catorce por ciento tanto del pib como del empleo y un sector que con esta dimensión está atravesando una situación realmente frágil si analizamos el periodo de la llamada crisis desde el año dos mil ocho al dos mil catorce vemos que en la comunidad autónoma vasca se han perdido

aproximadamente el diez por ciento del total y los establecimientos comerciales también han descendido en un número de cinco mil es decir

en este periodo de crisis los que sobreviven además están en una situación mucho peor que hace unos años y en algunas

economía de guerra luchando por la propia subsistencia el año pasado donde ya empezó

se redujo también en uno coma dos por ciento el número de puestos de trabajo en el comercio minorista algo más de un millar con un saldo negativo en cuanto al cierre de trescientos sesenta y seis establecimientos y en este año en este año que ya

tenemos que analizar que sí efectivamente se ha frenado

tampoco estamos en una situación que permita echar las campanas al vuelo estamos hablando de que lo que va de año hemos registrado un aumento

del comercio minorista que desde luego no es descender pero es una subida pírrica y es además bastante menos de lo que a principios de año

las expectativas por tanto nos encontramos con un sector importante para la economía que se encuentra en una situación muy crítica en cuanto a los datos de empleo y actividad

laburbilduko ditugu horietako batzuk tenemos que decir que esta ley

tiene origen en una imposición de madrid que no solo no se combate sino que se asume

además es una imposición que a día de hoy está recurrida por el propio gobierno vasco

adelantarse a esta resolución y en todo caso si la resolución fuera desfavorable a los intereses de esta comunidad habría que buscar mecanismos para hacer más leve el daño

y desarrollarlas y extenderlas como hace el gobierno vasco con esta propuesta de modificación de la ley de actividad comercial el cambio normativo como decía al principio solo afecta a las grandes superficies es decir esto es una norma para que las grandes superficies puedan abrir en determinadas fechas

porque las superficies comerciales de menos de ciento cincuenta metros cuadrados ya tienen a día de hoy esa posibilidad y no la ejercen de forma absolutamente mayoritaria salvo excepciones muy puntuales y no la ejercen porque a los pequeños no les resulta rentable

por el cambio serían las grandes superficies además tenemos que tener en cuenta que se está dando un proceso

al centro de las ciudades por lo que por tanto incluso se da el peligro de que aunque se acoten zonas urbanas para ser declaradas zonas turísticas dentro de esas zonas urbanas cada vez existan

el turismo es solo una excusa el sector turístico a día de hoy no necesita en absoluto y los datos por una vez estamos de acuerdo en que son

de gran bonanza y desde luego nadie se plantea a la hora de hacer un viaje mirar cuáles son los horarios de las tiendas

cultura fiestas tal y como dicen los expertos pero no desde luego horarios comerciales ni tiendas de lujo como les está pasando a algunos que pensaban que bilbao iba a ser

de campanillas en europa además hay normativas diversas pero prima el cierre en festivo en la mayoría de los países especialmente en los países del norte que

más que inviten a mantener las tiendas más abiertas o durante más tiempo en el verano

prima impera el cierre en festivos la norma no contempla una plena liberalización en eso estamos de acuerdo pero abre la puerta a una liberación parcial

por tanto consideramos que esta ley es una autentico caballo de troya para posteriores intentos y de prolongar sus efectos o ampliar

para la liberalización un portillo a la liberalización de horarios que no hay ninguna necesidad de abrir

que cualquier municipio de esta comunidad y bueno en la ley aparece la enumeración de requisitos pero por si fueran pocos al final pone cuando concurra circunstancias especiales que así son es decir es una ley omnicomprensiva unos criterios omnicomprensivos que permiten que cualquier municipio de la comunidad

estas zonas no van a aumentar el volumen de negocios sino que lo van a trasferir en el caso de que sean designadas no va a generar un nuevo volumen porque los turistas dejen más dinero sino lo que van a hacer es que las personas de aquí en esos festivos

desde la periferia desde los pueblos a unas pocas zonas en unos lugares concretos y además va a provocar un conflicto laboral

en dos zonas en dos capitales de este país zonas

en un conflicto interno con sus propios trabajadores y con los sindicatos que les lleva no solo a no utilizar esta opción sino a no abrir en los demás días festivos

hay una oposición sindical muy fuerte a esta cuestión y generaría un nuevo problema social afortunadamente los sindicatos y los trabajadores organizados han conseguido

en defensa de sus derechos en defensa de la conciliación pero aquí tendrían nuevamente un nuevo campo de batalla que no tenemos porque poner sobre ellos esta responsabilidad sino desde aquí ya tenemos cerrar esta puerta

la diferenciación la especialización en un comercio pequeño cercano y con personalidad es lo que nos puede dar un plus frente a un turista que contempla las mismas tiendas de grandes cadenas en cualquier lugar del mundo

en el pequeño comercio fundamentalmente su principal problema es de todas formas y evidentemente el descenso de la capacidad adquisitiva provocada por la crisis el paro

que son las que determinaran que el pequeño comercio salga adelante o no

del trabajo seguirá sucediendo que las personas que consumen la base que mantiene el comercio tendrán limitada su capacidad de gasto y por tanto el comercio seguirá

en la que se encuentra en estos momentos se pueden trabajar y se deben trabajar iniciativas de apoyo al comercio se debe hablar con el sector se deben fomentar mesas hay cosas que se están haciendo en la buena dirección en diferentes sitios hay bonos planes de formación planes de relevo hay que mejorar la oferta efectivamente

para mejorar y para defender el pequeño comercio pero desde luego una de esas cosas no es esta ley esta ley es innecesaria

y no resuelve ninguno nosotros y nosotras podemos resolver hoy

evidentemente quedaría trabajo por hacer evidentemente y como decía anteriormente hay una problemática socioeconómica integral que incide en la situación delicada en la que se encuentra el comercio

tengan unos salarios justos y que a raíz de ello puedan seguir consumiendo porque aquí no hay un problema de horarios como decía en otra intervención también sobre esta temática parafraseando una frase del quince mil aquella que decía que le sobra mes

pues aquí nos sigue sobrando tiendas abiertas cuando se nos acaba el dinero para consumir en ellas por tanto ahí hay que centrar la cuestión de hecho devolviendo esta ley al gobierno no habríamos resuelto el problema pero por lo menos habríamos dado un paso hacia ello o por lo menos habríamos evitado una nueva agresión

señorías buenos días los socialistas vascos presentamos esta enmienda a la totalidad y solicitamos la devolución al gobierno del proyecto de ley de tercera modificación de la ley de actividad comercial porque consideramos que este proyecto se basa en todo un compendio legislativo compuesto por un real decreto ley

y por la ley dieciocho barra dos mil catorce de quince de octubre que inciden en las materias de comercio y turismo sin respetar el ámbito competencial

el gobierno vasco tenía que haber recurrido el real decreto ley veinte barra dos mil doce de trece de julio como lo hizo con los preceptos del decreto ley ocho barra dos mil catorce de cuatro de julio ante el tribunal constitucional

y pensamos que debe esperar la resolución de esos recursos que también han interpuesto otras comunidades autónomas por las consecuencias que de los mismos pudieran derivarse

el relato de la influencia que ha tenido la aplicación de estas disposiciones del gobierno de españa en el país vasco es bien sencillo el real decreto ley veinte barra dos mil doce de trece de julio

entre las que destacaba la obligación para catorce ciudades de españa de designar zonas de gran afluencia turística

de este modo bilbao fue una de las ciudades forzadas a fijar dichas áreas dentro de su municipio los criterios para elegir estas ciudades ya los ha comentado la consejera

que tengan más de un millón de pernoctaciones de turistas al año

el resto de municipios que lo desearan también podían solicitar tener declaradas zonas de gran afluencia turística y lograr así horarios comerciales más amplios

es que las ciudades fijadas por ese real decreto del gobierno de españa quisieran sus gobiernos autonómicos o no estaban obligadas a disponer de esas zonas de afluencia turística

era un plazo de seis meses para comunicar qué zonas habían sido las seleccionadas además el gobierno de españa mediante el real decreto ley ocho barra dos mil catorce de cuatro de julio extendió a otras diez ciudades la obligación de designar esas áreas de zona de gran afluencia turística

abrir tener otros horarios más amplios horarios comerciales y días de apertura en este caso le tocó la lotería a donostia san sebastián ante esta situación el gobierno vasco procedió a la aprobación de dos resoluciones la de uno de septiembre de dos mil catorce de la viceconsejera de comercio y turismo por la que se hacía pública la declaración en el municipio de bilbao

y la resolución también la segunda fue la de once de diciembre de dos mil catorce

de gran afluencia turística en el municipio de san sebastián en ambos casos se hacía mención expresa y se justificaba esa medida en el artículo cinco de ese real decreto ley ocho barra dos mil catorce que establecía que si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos las comunidades autónomas competentes

en el municipio en el que concurran determinadas circunstancias se entenderá declarada como tal

las resoluciones conforme con lo dispuesto en esa disposición adicional undécima del real decreto ley veinte barra dos mil doce

los meses de julio y agosto de dos mil quince para ambas ciudades tanto para bilbao como para san sebastián y decía la consejera que

la modificación legal que traía aquí que era el mal menor y no señora consejera son las resoluciones que sacó la viceconsejería de comercio y turismo

de todas las disposiciones normativas del gobierno de rajoy que pretenden una extensión y una ampliación de los horarios y de los días de apertura

los socialistas ya planteamos en su momento una serie de enmiendas a ese real decreto ley ocho barra dos mil catorce de cuatro de julio porque considerábamos que las medidas sobre horarios comerciales

no habían sido consensuadas ni con las autoridades competentes encargadas de su aplicación efectiva

económicos afectados además supone un vaciamiento de competencias de las comunidades autónomas en materia de comercio interior y es claramente contraria a la jurisprudencia del tribunal constitucional con la última reforma del gobierno de españa con esa ley dieciocho barra dos mil catorce de quince de octubre se obvia clara

la competencia que tiene el gobierno vasco en materia de comercio interior y se obvia también claramente su capacidad para diseñar la política comercial que considera adecuada a la realidad socioeconómica de euskadi tal y como se recoge en el artículo diez punto veintisiete

señora consejera donde los socialistas consideramos fundamental primero los recursos de inconstitucionalidad segundo preparar una regulación del comercio vasco que sea consensuada que sea pactada por cierto un término que últimamente se utiliza mucho que sea consensuada y pactada con los principales agentes del sector

existente porque la hay y que sirva para que realmente el comercio vasco pueda aprovechar todo el ámbito de oportunidades que la coyuntura económica pueda plantearle

el turismo por qué no en todos los debates que hemos tenido los socialistas vascos tanto en esta cámara como en los ayuntamientos donde se ha tratado la vinculación comercio

hemos instado e insistido para que la regulación que se llevara a cabo desde el gobierno vasco en el ejercicio de sus competencias fuese una regulación consensuada entre las instituciones y los agentes sociales y sindicales del sector comercial vasco en el caso que hoy nos ocupa ha resultado más que evidente tras las diversas manifestaciones realizadas en el parlamento vasco por comparecencias de gente pertenecientes a diversos organismos entidades asociaciones y organización sindicales

dos largos días que además de no resultar el comercio fueron las conclusiones una materia pacífica eso sí se concluyó se producía en el propio sector

a esta regulación un rechazo más que significativo aquellos dos días sirvieron para establecer que las posiciones de las partes afectadas estaban muy alejadas

un mínimo consenso o satisfacción de intereses sino que además

no responde señora consejera a las necesidades prácticas y reales las asociaciones las federaciones los sindicatos en definitiva el sector comercial tampoco son del interés general de los y las consumidoras porque algunas de sus organizaciones también tuvimos oportunidad en esos dos días de comparecencias

algunos contrarios a la regulación que se pretende impulsar por el gobierno vasco la memoria económica elaborada para la tramitación de esta modificación de ley tiene como base un documento

en la distribución comercial minorista del país vasco que es considerado este documento por el sector como un documento inexacto parcial y desconocedor de datos objetivos sobre el flujo económico general en euskadi la modificación legal que se propone y que se defiende por sus autores en la vinculación entre el comercio y el turismo

objetivos esta vinculación y la captación del incremento del gasto turístico por la actividad comercial

explica ese documento es la captación que se produciría del gasto público del área de influencia en el país vasco al que se trata como turista en definitiva y en román paladino que los estudios que avalan el proyecto

a esta cámara consideran el comercio interior vasco todo el comercio interior vasco como el comercio turístico y este hecho desvirtúa la derivada consecuencia

estos estudios además no detallan los sectores que realizarían la captación del gasto no distinguen el formato comercial y parten de la base errónea de contemplar la apertura comercial en domingo y festivo como algo novedoso en euskadi

obviando el hecho de que los establecimientos menores de ciento cincuenta metros cuadrados ya pueden abrir legalmente en domingos y festivos una práctica que en algunas ciudades de euskadi sí se viene realizando y en otras no y en estos estudios que avalan esta modificación de ley

abren los comercios y en otras no los domingos y festivos y tampoco explican los motivos por los que aquellos comercios

sí lo harían si se aplica esta ley cuando se aplica la ley a comercios

por lo tanto no es de aplicación a los de menos de esa superficie y tampoco explican esos estudios las consecuencias de esta aplicación de la modificación de ley

está la disposición normativa que posibilita en euskadi la apertura de ocho festivos y esta disposición normativa no se aplica en todos los casos

que este proyecto de ley que hoy se trae aquí de modificación de la actividad comercial no solo no va a regular alegal porque efectivamente disponemos hoy de normativa propia en euskadi sino que su aplicación pueda acrecentar la conflictividad que existe en el sector

de los municipios que no tuviesen la condición de turísticos hacia los que sí fuesen así considerados conforme a los criterios que se exponen en este proyecto de ley

no sospechosos respecto al comercio minorista y las consecuencias de la aplicación de la liberalización horaria o de la intensidad regulatoria

que no se encuentran indicios suficientes para afirmar que la liberalización de horarios comerciales provoque los efectos esperados ni en aumento de la cifra de negocios

así por ejemplo si tomamos el referente madrileño un año después de la entrada en vigor de la liberalización total de los horarios

el resto de comunidades autónomas que tenían una regulación comercial más restrictiva y además presentaba mayores contracciones del empleo cuando sin embargo

un equilibrio en su aplicación y unas claras ventajas generales para todo el sector

pero hemos podido percibir que las ventajas de esta modificación legal que se propone no son en absoluto claras para el conjunto del país vasco ya que la aplicación y el desarrollo de la actual normativa no está generando problemas o conflictos en el conjunto de euskadi en cambio la nueva regulación que se nos propone

o el consenso entre el propio sector comercial y no hay ninguna previsión de pactos o acuerdos con los agentes sindicales lo que plantea ya de inicio una previsión de problemas

la modificación que se propone pretende un fortalecimiento del comercio a través del turismo pero es previsible que sus consecuencias sean las contrarias si no se establecen medidas de protección e impulso al pequeño comercio ya que al aplicarse para superficies mayores de ciento cincuenta metros cuadrados

quedando el pequeño comercio tanto de las zonas consideradas turísticas como el de las que no fueren así consideradas

en su captación de gasto euskadi tiene competencias exclusivas en materia de ordenación comercial y las medidas de ordenación y regulación de la actividad comercial deben servir para determinar el modelo a desarrollar en el conjunto del territorio

en euskadi una regulación comercial que vaya contra el propio sector sino que planteamos la transposición de otras experiencias que las hay en europa donde la regulación comercial contempla y se basa en variables como la conciliación laboral y familiar la sostenibilidad medioambiental o el equilibrio territorial pensamos que hay un trabajo de gestión por parte del gobierno vasco

con todos los agentes del sector comercial para buscar esos consensos esas complicidades en todo euskadi en ese sector para lograr un futuro próspero

buscamos y pretendemos pero señorías visto y oído lo que las partes nos han estado exponiendo

entendemos que el ámbito legislativo debe ser el último peldaño a subir para que se ratifique un acuerdo y las posiciones consensuadas

el elemento que genere desencuentros y conflictos y esto parece que está anunciado con esta modificación de ley nada más y muchas gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías efectivamente para de manera breve explicar nuestra posición contraria a las enmiendas de totalidad el reto

en el sector del comercio de la actividad comercial de la distribución comercial ha sido

la modernización modernizar especialmente comercio minorista ayudarle acompañarle en esa modernización en ese necesario proceso de adaptación a las nuevas realidades y desde el partido popular desde luego para eso está la hemeroteca hemos siempre

en la necesidad de proteger al pequeño comercio al comercio minorista tradicional

ese equilibrio entre lo que tiene que ser nuestro preservar ese tejido que hacía propio de nuestra comunidad

comercios por cada mil habitantes francia tenía siete nosotros teníamos trece un tejido comercial que nosotros entendíamos que debíamos proteger

exigía necesariamente tratar de buscar ese equilibrio entre el comercio minorista y las nuevas formas de distribución en aquel momento

llegada a nuestra comunidad de los grandes centros comerciales de las grandes cadenas en su momento

de las propias franquicias y marcas en cada uno de los sectores más tarde las medianas superficies que llegaban al centro de las ciudades ya no era

se introducían en el centro de las ciudades y posteriormente la venta por internet y otras formas de negocio que hoy efectivamente afectan

la distribución y la actividad comercial en nuestra comunidad y en todo el mundo distintas modificaciones de la ley

permitiendo entre otras cosas ampliar la capacidad de decisión y ahí sí que nosotros hemos defendido siempre ir ampliando la capacidad de decisión de los comerciantes del pequeño comercio sobre sus horarios las aperturas en festivos etcétera darle capacidad para decidir

no para decidir bajo presión de los sindicatos no para en libertad en el país vasco durante todos estos años

nunca han abierto y han tenido la posibilidad de hacerlo y ahora me choca la posición del partido socialista porque mi primera intervención en esta cámara en el año mil novecientos noventa y seis ya han pasado algunos años fue para defender

la protección en relación con los horarios

era una consejera socialista la que defendía la libertad total de horarios era una consejera socialista la que defendía esa libertad total de horarios hace ya veinte años

pacto tácito al respecto y desde luego han sido reales decretos de

los que determinan esos criterios para que los municipios o alguna zona concreta de los mismos de determinados municipios

facilitar de esa manera la capacidad de negocio a toda empresa

posibilitar una regulación que amplíe esa capacidad de decisión de la que hablaba

en su negocio y que considere oportuno esa regulación debe dar respuesta a nuestro juicio

va viene estamos convencidos a redundar en un impulso también del propio sector turístico pero también del sector comercial y además siempre hemos defendido una ciudad viva una ciudad abierta

mucho más atractiva no supone un problema a nuestro juicio es claramente una oportunidad el sector comercial especialmente el minorista

que le ofrece el sector turístico supone efectivamente creemos una gran oportunidad que se puede aprovechar de manera positiva en relación con las enmiendas y de manera breve las enmiendas del psoe

al descubierto que no sabe por dónde le da el aire no sabe por dónde le da el aire en materia de comercio da

nunca ha tenido un discurso realmente constructivo en materia de comercio no tiene ni idea de lo que necesita

en materia de actividad comercial pero es que tampoco saben por dónde les da el aire en materia de definición de lo que son las competencias las competencias del estado y las comunidades autónomas

cuando ustedes saben perfectamente que el estado también tiene competencias en materia de unidad de mercado por supuesto que sí ustedes subordinan la tramitación de la ley a un supuesto hipotético recurso

ha interpuesto un recurso pero que no afecta a la parte que se trae hoy aquí a debate no afecta y el gobierno no va a recurrir esa parte

esas zonas de gran influencia turística no lo va a hacer luego esto es humo y desde luego los diputados socialistas oiga con cincuenta diputados en madrid y ustedes tienen ciento y pico podrían haber recurrido esta ley y no lo han hecho porque su grupo

de que esta ley es plenamente constitucional y no invade competencias porque la constitución

que la planificación de la actividad económica es competencia exclusiva del estado es una cuestión señores socialistas

no solo de criterios de oportunidad y de competitividad

y seguramente con la ideología bildu nos dibuja un panorama

con un discurso absolutamente antiguo se reproduce aquí los debates del comercio de hace veinte quince años oiga han cambiado mucho las cosas mire

yo tengo una tienda de ropa no podríamos tener aquí como las farmacias o como los bares que me limiten que no pueda haber ninguna tienda de ropa en

es bueno y de repente se descubrió que había centros comerciales

los debates en relación con la distribución comercial han cambiado mucho no se puede sustentar toda su oposición a este planteamiento en una posible capacidad

los puestos de trabajo que usted dice que se han perdido o los miles

se han cerrado en una situación de limitación total de horarios nadie abría en domingo aquí y se han cerrado comercios

en madrid donde sí se abrían ha descendido en la misma proporción no en una proporción superior luego no altera la libertad no altera la libertad de horarios da

a los comerciantes a aquellos que en función de su situación consideran que tienen una mejor oportunidad una mejor oportunidad para sacar adelante su negocio

he sido comerciante durante muchísimos años oiga muchos pueblos

muchos comercios de vitoria se han venido beneficiando de las compras de muchos clientes

que le abramos las tiendas los domingos vienen los sábados oiga si se abren las tiendas los domingos o

de horarios lo estamos planteando para conseguir captar negocia de esos seiscientos mil turistas que lo están demandando

que pueden que pueden fortalecer al pequeño comercio
en bilbao en san sebastián o en aquellos municipios donde los comerciantes lo consideren oportuno nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

pero usted señora corcuera toma la parte por el todo dice algunos todo el sector

algunos todo el sector y desde luego si sus estudios que también es un estudio de parte se parecen a aquel estudio que usted defendió sobre los alquileres de los comercios pues la verdad es que el rigor yo creo que brilla por su ausencia

eta hori da perspektiba en relación al partido socialista

los campeones ahora del autogobierno pero quién estaba en el año dos mil doce en el gobierno señora corcuera

del mes de julio el veinte barra dos mil doce del mes de julio quién estaba en julio del dos mil doce en el gobierno otra vez nuevamente exigen a los demás lo que ustedes no hacen por qué no lo recurrieron ustedes

del dos mil trece entró en funciones y este decreto dos mil doce intentando mostrar que son los campeones de la defensa del autogobierno se aprobó en julio de dos mil doce cuando ustedes estaban en el gobierno y no lo recurrieron y

obvian sorprendentemente la aplicación práctica de todas estas disposiciones contenidas en el proyecto de ley

el mecanismo es algo absolutamente claro se tiene en cuenta a los ayuntamientos y al sector comercial a la hora de declarar

en un determinado periodo de tiempo y en una determinada zona de la ciudad o el municipio en cuestión

no parte del gobierno vasco no lo impone el gobierno vasco parte del ayuntamiento que en sesión plenaria por mayoría debe de solicitar al gobierno vasco la declaración de gran afluencia turística para determinadas zonas y para determinados momentos del año

sino que lo debe de hacer después de escuchar al sector comercial eso no es consenso por qué han obviado ustedes explicar todo este mecanismo de aplicación que precisamente incide en el consenso en tener en cuenta

en tener en cuenta a los ayuntamientos yo les digo una cosa si algún ayuntamiento aprovechando la aplicación de esta modificación de ley

de gran afluencia turística podemos estar muy tranquilos de que está

esto no son medidas unilaterales este proyecto de ley y la voluntad del gobierno vasco es contar con los ayuntamientos y con el sector comercial

como decía antes antes de la tramitación de este proyecto de ley en las consultas preceptivas e insisto que no se me puede tomar la parte por el todo

usted ha afirmado aquí que el sector comercial no no

del sector comercial y tampoco me ha hablado de la opinión de eudel que creo que es importante bueno por todo lo cual

estas dos enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley y esperamos que sean efectivamente rechazadas y a partir de ahí tendremos

ocasión de hacer lo que no han hecho ustedes alejándose de planteamientos teóricos o prospectivos señor casanova que pueden estar bien hausnarketa egin beharra dago bai pero fijarse un poco en el contenido concreto del proyecto

que con lo cual se comprobará que muchas de las críticas reservas que tienen en mi opinión quedan muy disipadas

leyes adelante que todavía hay una bolsa importante de leyes que no se han resuelto yo voy a hacer una propuesta para acelerar los ritmos en este parlamento vamos a trabajar los domingos habilitamos los domingos para venir aquí a discutir de todo este tipo de cuestiones no verdad no nos gustaría

a levantar la persiana no les gusta porque tienen vida porque tienen familia y porque les gustaría pasar su tiempo de ocio con su familia porque aquí muchos hablan mucho

pero no sé qué modelo de familia defienden si lo que quieren que uno de los progenitores esté en la tienda trabajando y el otro se vaya a finlandia si es allí donde tiene una oferta de trabajo

hay que respetar también la existencia de un tiempo de ocio eta guk uste dugu gaur egun probatuta dagoela

legislaciones más agresivas que puedan venir desde madrid que es mejor regularlo ahora porque luego pueden venir con otra imposición da igual lo que regulemos aquí

da igual qué normas tengamos aquí da igual los decretos las leyes el estatuto de autonomía da igual cuando venga madrid con la imposición vendrá madrid con la imposición

eso es a día de hoy el entramado jurídico que tenemos en este país un escudo de papel porque cuando viene madrid con la imposición no queda otro remedio que asumirla o acatarla o bien

en esa tesitura precisamente nosotros unos nos dicen no es que esto es para aprovechar los turistas

es para aprovechar los que vienen y que gasten aquí bueno se han puesto sobre la mesa

ni van a venir más turistas ni van a hacer más gasto porque el volumen de turistas que vienen aquí que por cierto estamos hablando de uno de los siete días de la semana estamos hablando de los domingos

para gastar y como decía antes esa oferta está perfectamente

está perfectamente satisfecha con los horarios actuales nosotros apostamos por un modelo de turismo que venga que enriquezca que aporte dinero

a cambiar todos los hábitos a cambiar toda la sociedad a cambiar todo nuestro modelo para en una sociedad exclusivamente dependiente que incluso nuestros horarios y nuestros ritmos de vida se tenga por qué adaptar

pero no hay por qué renunciar a nuestro derecho al descanso al ocio y a la conciliación familiar por el turismo no es necesario y además no tiene ningún sentido porque no produce ninguna rentabilidad

algunos comercios que están en el borde de la supervivencia esto les podría dar un empujón
hacia el abismo eskerrik asko casanova jauna

sí gracias presidenta bien hoy hemos planteado una enmienda a la totalidad para devolver este proyecto de ley

porque entendemos que no se debe plantear una ley sectorial contra la mayoría de los agentes de este sector contra la mayoría señor

lo que a mí me parezca el total la parte o lo que usted quiera por tanto

a nuestro modo de ver contra la mayoría de los agentes del sector que son los que se han manifestado durante dos días en esta cámara en las más diversas comparecencias

también al real decreto ley del dos mil catorce y a la ley dieciocho barra dos mil catorce que bajo el paraguas de las más diversas medidas

y el nombre del crecimiento la competitividad y la eficiencia imponen al sector del comercio la determinación de zonas de gran afluencia turística imponen su ámbito imponen su temporalidad y vacían de competencias la capacidad de nuestra comunidad autónoma para la ordenación y la regulación de la actividad comercial

defensores del autogobierno los socialistas vascos faltaría más entendemos que además hay que devolver este proyecto de ley porque no hay indicadores solventes indicadores suficientes en los estudios que se han realizado sobre este tema de la liberalización de horarios y de aperturas

entre la desregulación y el aumento de la cifra de ventas ni en el empleo ni en la eficiencia del sector

explican que la regulación versus la liberalización de horarios comerciales manifiesta sus efectos en mayor medida sobre la estructura comercial sobre el número de puntos de venta y el tipo de formatos en lugar de sobre la actividad económica el empleo y la eficiencia del sector que son los términos que apoyan

sacados por el gobierno del señor rajoy en el programa del gobierno vasco para esta legislatura se plantea

la actualización del marco regulatorio del comercio y plantea la siguiente iniciativa promover iniciativas con la participación de los diferentes agentes del sector comercial vasco para mejorar la actual normativa del comercio en defensa de los intereses del pequeño comercio

que si la participación es algo más que el sentirse escuchados que el sentirse oídos ustedes saben que esta modificación de ley que hoy plantean no cumple

en el programa de gobierno del gobierno vasco por tanto yo recomendaría prudencia y sí señor oyarzabal prudencia

muy poco riguroso y usted lo sabe cuando habla de por qué no hemos recurrido cómo que no han recurrido los socialistas en comunidades autónomas

porque precisamente esos reales decretos leyes lo que hacen es vaciar de competencias autonómicas vaciar de competencias autonómicas sea usted riguroso

y es más señor oyarzabal si se mira algún diario de sesiones del congreso de los diputados podrá comprobar como el grupo socialista ha planteado y planteó en su momento

cuatro cinco seis siete y anexo primero del real decreto ocho barra dos mil catorce de cuatro de julio por eso le pido rigurosidad

se lo puede usted guardar en la cartera porque sabemos muy bien los socialistas

nos hacen ustedes tantas nos hacen llevar al tribunal constitucional tantísimos recursos que claro ya uno más igual a usted se le va pasando o no lo tiene en cuenta

por diversas comunidades autónomas gobernadas por socialistas y

usted sabe que hay un proceso para poder recurrir para poder llegar ante el tribunal constitucional y sabe usted cuándo fueron las elecciones autonómicas en euskadi

prudencia devolver este proyecto de ley al gobierno y aprovechar la coyuntura para gestionar la búsqueda de consensos y acuerdos con todos los agentes del sector encontrando el encaje de las variables como la conciliación laboral y familiar y la sostenibilidad medioambiental como ocurre en otros países

en esos pactos regulatorios porque así conseguiremos que este papel legislativo que hoy se supone que debemos de hacer aquí que nos toca jugar en esta cámara sea realmente

útil y no un elemento que al aplicarse provoque desencuentro y conflictividad y a la mayor parte del sector va a provocar desencuentro

mire llevan ustedes varios años diciendo que quieren cambiar la constitución no nos han dicho exactamente qué es lo que quieren cambiar está muy bien que nos vayamos enterando que igual lo que quieren cambiar es este tipo de cosa dar más competencias romper la unidad de mercado

de la constitución porque mire en correspondencia con el presupuesto de un único orden económico nacional y la consiguiente existencia de un mercado nacional único

sentencia del tribunal constitucional señora corcuera se entiende la competencia estatal se extiende

siempre que para la necesaria coherencia de la política económica general sea preciso adoptar decisiones unitarias sentencia del tribunal constitucional señora corcuera la competencia estatal en cuanto a la ordenación de la economía

los objetivos de la política global o sectorial fijados por la propia constitución así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos

vamos a ver el tribunal constitucional habla que efectivamente aun existiendo competencias sobre un subsector económico en una comunidad autónoma

en relación con el comercio una comunidad autónoma que ha asumido como exclusiva en su estatuto

no excluye sentencia del tribunal constitucional no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector

la constitución reserva al estado esa capacidad y no excluye esa competencia de establecer bases de coordinación

y que el ejercicio autonómico de esa competencia exclusiva puede estar perfectamente condicionado por medidas estatales y

ustedes son los que ahora tendrán que explicar exactamente hacia dónde quieren llevarnos hacia dónde

nosotros entendemos que perfectamente es compatible respetar las competencias de la comunidad autónoma de las comunidades autónomas con buscar también coherencia

económica en nuestro país y garantizar también la unidad de mercado de nuestro país es algo que defendemos mire usted dice que no hay indicadores que ratifiquen si esto es bueno o no sí los hay sí los hay y la libertad

lo que ha generado según todos los estudios es mayor empleo y desde luego más oportunidades al desarrollo

formatos de comercio también del pequeño comercio pero además estamos ante un debate falso estamos ante un debate falso

deberíamos hacerlo hoy que hoy existe libertad de horarios no estamos aquí debatiendo sobre

en nuestra comunidad cualquier comercio que tenga hasta ciento cincuenta metros hasta ciento cincuenta metros de superficie de ventas

y abren aquellos que lo consideran oportuno aquellos que lo consideran oportuno oiga los que no tienen ninguna necesidad de abrir no abren aquellos que claro los que quieren descansar los domingos

aquellos que su negocio depende de trabajar unas horas más

hemos prohibido que los hosteleros tengan vida familiar aquellos comercios que abren

no se genera empleo se generan nuevos empleos

se generan nuevos empleos en el comercio como se generan en la hostelería se generan nuevos empleos

no hablamos de obligación para abrir hablamos de capacidad de decisión para los pequeños comerciantes

para tomar sus propias decisiones en realidad en relación con las oportunidades de negocio queremos aprovechar las oportunidades de negocio sí o no a esos turistas que usted dice señor casanova que quiere usted que vengan aquí los turistas a generar riqueza y negocio qué les ofrecemos

los pintxos a tres euros y las coca colas a seis que se ofrecen en algunos lugares de nuestra comunidad

a aprovechar esas sinergias del turismo no tienen derecho muchos comerciantes en función de dónde están localizados sus comercios para aprovechar las oportunidades de negocio

no tienen derecho a eso tenemos que obligarles a cerrar o tenemos que obligar a los vascos que

a hacerlo como les vemos hacerlo a los vascos en cantabria en

oiga estamos hablando de libertad de libertad no de obligaciones

no creo que esté en contra y en todo caso tampoco se me escude por favor en cuestiones de calendario para constatar ustedes no recurrieron el decreto de dos mil doce que ahora piden a este gobierno que lo haga y eso es una incoherencia y por lo menos lo que podía hacer es reconocerlo y termino tanto para el señor casanova como para la señora corcuera subrayando nuevamente este proyecto de ley y es la intención de este gobierno el adaptarlo a la situación de nuestros sectores turístico

además de contar con el máximo consenso a la hora de aplicarlo y es que me parece esencial me parece esencial atender al mecanismo

pero sí que quiero insistir en que tiene en cuenta a los ayuntamientos y tiene en cuenta al sector comercial de cada municipio en cuestión por lo tanto supone y ofrece las garantías suficientes de consenso y de que si existe una petición

que es zona de gran afluencia turística y por lo tanto los comercios pueden abrir

del gobierno en fin creo que los grupos que han intervenido durante el debate de este asunto han explicado perfectamente

y creo que han dado su punto de vista sobre la cuestión y creo también que todos ellos han dicho cosas interesantes que podemos compartir

intención al menos inicial en este caso ya digo que vemos argumentos consistentes tanto en unos grupos como en otros grupos y de ahí

voy a tratar de dar las razones por las cuales finalmente me he abstenido hay una normativa estatal en vigor cuestión de la liberalización de los horarios comerciales y sobre ella ya nos posicionamos en el congreso de los diputados con las correspondientes enmiendas si no se aprueba una normativa vasca y en concreto el proyecto de ley presentado por el gobierno vasco se aplicaría directamente la normativa estatal

a día de hoy nos obliga por otro lado este proyecto tampoco aporta excesivas novedades además de las enmiendas de totalidad

la falta de consenso suficiente el rechazo a la ley de las principales asociaciones y sindicatos

importante los conflictos laborales que podrían generarse

al pequeño comercio pero otros argumentos los rechazamos en concreto las referencias a la vulneración del autogobierno a la imposición de madrid o al alegato digamos exagerado contra las maldades de liberalismo

especialmente del grupo eh bildu además pensamos que devolver sin más este proyecto al gobierno vasco no solucionaría nada de lo que ambos grupos han señalado

en el texto legal quizás lo mejor sea trabajar para ello en la ponencia en el caso concreto del grupo socialista propone y exige consensos con el sector y creo que ese consenso puede buscarse y alcanzarse en la ponencia y es lo que nosotros nos proponemos hacer ponencia por tanto lo más razonable en nuestra opinión es que se ponga en marcha cuanto antes la ponencia y que en ella seamos capaces de confeccionar el mejor texto legal posible y que tenga el consenso más amplio agentes del sector comercial incluidos el texto planteado por el gobierno vasco tampoco lo compartimos en su totalidad

redactado es mejorable a pesar de que teníamos redactadas varias enmiendas parciales finalmente decidimos no registrarlas a la espera de acontecimientos

óbice para que upyd trabaje en la ponencia y plantee sus propuestas y reivindicaciones en conclusión veo que es mejor que continúe el proceso y que seamos capaces de elaborar en la ponencia la mejor ley posible teniendo en cuenta evidentemente los márgenes que tenemos las reivindicaciones del sector y los intereses de todas las partes afectadas escuchados hoy los argumentos de los diferentes grupos me parece que podría haber margen suficiente para el consenso y para el acuerdo y es al menos lo que nosotros trataremos de hacer devolver el proyecto de ley al gobierno vasco no veo que solucione nada

al texto que salga de la ponencia dependerá de cuál sea

nuestra abstención por lo tanto permite que siga el debate parlamentario que siga el proceso parlamentario

que la ley vaya a salir adelante al menos por lo que a nosotros

o mucho mejora en la ponencia o votaremos en contra de la ley en todo caso como digo y otros grupos también han dicho creo que hay margen suficiente para el consenso y el acuerdo por nuestra parte por lo tanto vamos a intentarlo

ongi etorria eman nahi diegu en primer lugar queremos dar desde el grupo popular la

más justas y también mostrar nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado

queremos agradecer a los miles de ciudadanos sin ideologías de diferentes ideologías ciudadanos

sin etiquetas que hoy están presentes en la toma en consideración de esta iniciativa gaur debate honetan

hoy se trata de abrir un debate sobre una cuestión que inquieta a muchas personas y que se refleja en esta iniciativa

aquellos que somos sus legítimos representantes políticos personas que no podemos ignorar y que tenemos el deber de escuchar

hoy no podemos dejar de oír a cuarenta mil conciudadanos

de mejorar y reforzar el sistema de protección en euskadi

que quieren que se garantice un sistema de protección más equitativo más justo más solidario y más sostenible

no solo de españa sino del resto de europa el gasto en euskadi representa el cuarenta por ciento del gasto

de inserción es uno de los sistemas más solidarios con las personas en situación de necesidad

comparamos con los sistemas de otras comunidades autónomas la mitad del presupuesto como sabe bien este gobierno el lehendakari

la mitad del presupuesto del departamento de empleo y políticas sociales

sociales por lo tanto la solidaridad y la justicia social son principios que constituyen nuestra seña de identidad

ikurrak y es precisamente en los momentos de crisis económica de mayor dificultad económica cuando aumenta el número de perceptores y en consecuencia incrementar los recursos públicos para atender las necesidades existentes el sistema de protección social es imprescindible es indispensable como herramienta de cohesión social y lucha contra la pobreza es en estos momentos decía de crisis económica

el estado de bienestar y las administraciones públicas en consecuencia deben velar por que los recursos se destinen de forma eficiente de forma correcta y lleguen realmente a las personas que lo necesitan

por evitar las situaciones abusivas por salvaguardar los derechos de los más débiles y que se corrijan las deficiencias detectadas

mejorar el funcionamiento del sistema la existencia de fraude de abusos es la mayor muestra de insolidaridad por ello es obligación de los poderes públicos arbitrar los mecanismos necesarios

reforzar los mecanismos de solidaridad pasa por extender la protección a aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y que no pueden entrar en el sistema por tener por ejemplo un patrimonio de escaso valor

una sociedad con verdadera vocación solidaria debe hacer un esfuerzo por seguir ayudando a las personas mayores aquellas sobre las cuales

de muchos de sus familiares la solidaridad también es dar una oportunidad hacer efectiva la posibilidad de encontrar un trabajo

tras las declaraciones vertidas por miembros del gobierno y del propio lehendakari problema para aceptar el inicio de este debate el debate sobre este asunto comenzando con la toma en consideración de esta propuesta eso sí convendría poner encima de la mesa que ustedes empezaron rechazando cambiar el sistema

ante la evidencia de los datos que ustedes mismos querían esconder las personas irregulares que estaban cobrando la renta de garantía de ingresos los casos de fraude que se iban conociendo el número de cobros indebidos las situaciones de personas que se quedaban fuera del sistema y que eran realmente injustas el señor aburto el

decía que era necesario al principio no luego ya lo decía es necesario mejorar el sistema vasco de prestaciones sociales mostrando su disposición a reflexionar

usted señor toña que le cogió el relevo al señor aburto

y el lehendakari también nos ha dicho que es necesario incrementar el control sobre las ayudas sociales y que más control en las ayudas sociales es más justicia social

que obviamente como estamos en la toma en consideración en la apertura de un debate no son definitivas la inclusión de requisitos de la residencia legal y efectiva

que tienen que ver con el empadronamiento y la vida laboral previa hacer incompatible la percepción de la renta de garantía de ingresos con la comisión de delitos contra la sociedad precisamente esa sociedad que les está apoyando

revisar los requisitos de empadronamiento cuando alguien está en posesión de un bien de escaso valor aparte de la vivienda habitual y queda automáticamente

ampliar la cobertura a las personas mayores en casos de pobreza energética arbitrando para ello un complemento en las prestaciones que ya reciben

no podemos compartir el criterio desfavorable del gobierno

utilizados los argumentos pírricos utilizados por llamar de alguna forma argumentos ez dugu bat egiten gobernu honek

argudioak deitzen badiogu no se trata señor lehendakari

como se dice en ese criterio desfavorable parece ser que ustedes siguen sin entender nada o quieren seguir sin entender nada precisamente señor lehendakari es lo contrario ustedes quieren hacer oídos sordos

de miles de ciudadanos que quieren un sistema más justo que proteja los derechos de los más débiles y corrija las injusticias que impide reforzar en momentos de especial dificultad kontua ez da sisteman sartzeko baldintzak gogortzea

hutsik kontrakoa da por cierto ciudadanos a los que se les escuchó en otros momentos cuando plantearon

similares sí señor lehendakari usted no estaba en ese momento como lehendakari pero quiero recordar que estaba como parlamentario en esta cámara cuando se tomó en consideración la iniciativa para una carta de derechos sociales una vez en el año noventa y seis otra vez en el año noventa y ocho

cuando se tomó en consideración alguna otra iniciativa similar en relación a fortalecer los derechos sociales por lo tanto ustedes han tomado en consideración iniciativas similares en esta cámara planteadas por los ciudadanos porque ha sido a través de los ciudadanos

como se han impulsado muchos de los cambios realizados en las normas de contenido social gaur isilik utzi nahi dituzuen pertsonek

aldaketak bultzatu dituztenak ciudadanos que posiblemente estaban y están más a la vanguardia

a la realidad cambiante y a los nuevos tiempos ustedes que tanto hablan de diálogo de consenso

que no hay día que no hablen y me refiero al resto del arco parlamentario que algunos lo llevan en todas las páginas de su programa electoral que alguno los ponen como apartado ejemplar en todas las leyes que se traen a este parlamento como fue la ley de administración pública aunque tuvieron que retirarla por falta de apoyos

de participación ciudadana no pueden impedir hoy con su voto que los ciudadanos

señorías porque no sería coherente sería una gran contradicción prediquen con el ejemplo señorías en este parlamento siempre

iniciativas de contenido similar no hay precedentes delo contrario

ezin duzue gaur zuen botoekin herritarrak alde batera utzi ustedes hoy van a caer en un claro ejercicio

política ustedes que a la vez ustedes que a la vez están impulsando cambios

vigente en relación a la iniciativa legislativa popular para reducir los requisitos de las firmas que son necesarias reunir quieren reducir sí señora gorospe no se ría porque no me imagino que sea una cuestión para reírse simplemente por respeto a los miles de ciudadanos que han

que apoyan sus siglas es un claro ejercicio de hipocresía política que ustedes estén planteando

como dicen ustedes en ese dictamen que ya hay de la modificación de la iniciativa legislativa popular para acelerar las instituciones a los ciudadanos y propiciar o facilitar su participación en todos los asuntos que les conciernen es que ustedes quieren hacer eso ustedes quieren

restrictivo que se puedan proponer iniciativas cómo se puede casar todo eso

con la actitud que hoy van a tener ante esta iniciativa legislativa popular

de ciudadanos vascos ustedes también en el fracking en el criterio del fracking ustedes

que reconocían el valor de la iniciativa popular presentada y el amplio debate social existente en relación con la materia objeto de la proposición de ley y que consideraban por lo tanto oportuno

órgano por excelencia encargado del ejercicio de la iniciativa legislativa pero cómo pueden decir esto en el criterio del gobierno hace unos meses

firmas de los ciudadanos vascos con una cuestión de actualidad con un amplio debate con una cuestión que ustedes que han reconocido que hay que cambiar

se negaron pero después ante la evidencia de los datos tuvieron que claudicar

de hoy dar un portazo a miles de ciudadanos cuando plantean una cuestión que preocupa a los ciudadanos como también preocupaba por cierto la cuestión del fracking señorías hoy no pueden desoír la voz

que simplemente quieren mejorar el sistema de ayudas sociales en el que se dan situaciones injustas y presenta deficiencias manifiestas

de terquedades políticas y simplemente quieren cambiar las cosas que ven que no funcionan hoy tenemos la oportunidad de abrir un camino para la reforma del sistema de protección porque señorías hoy como tantas otras veces como tantas veces que hemos dicho que sí

de contenido social en otras iniciativas en esta cámara

luego vendrá el debate luego vendrá las propuestas de los grupos a través de las enmiendas y luego finalmente después del debate vendrá un texto que se someterá a la aprobación de esta cámara ustedes negándose hoy a iniciar el debate

apelan a una mayor justicia social y señorías creo sinceramente y desde el grupo popular lo creemos que es de justicia y nuestra obligación

a los ciudadanos y subsanar aquello que no funciona porque para eso hemos sido elegidos ezin dugu atzera bota

esandakoa porque legitimar el sistema es precisamente cambiar aquello que es susceptible de mejora y además cuando se tiene
el aval de tantos ciudadanos no se puede señorías poner ninguna excusa eskerrik asko eskerrik asko

en primer lugar quiero decir que me habría gustado que los promotores de esta iniciativa y los miembros de la plataforma ayudas más justas hubieran tenido la posibilidad de defender su iniciativa

cosa que venimos defendiendo desde el año dos mil nueve es decir que todas aquellas ilp puedan ser defendidas por los que dichas iniciativas desde la propia tribuna que tengan esa capacidad y debatir con el resto de grupos sus propuestas esto es algo que posiblemente se vaya a modificar en el futuro más o menos inmediato hay una proposición

ilp que además de proponer una reducción en las firmas necesarias para poder registrar una iniciativa legislativa popular también se plantea que

no solo en la presentación de la iniciativa en la propia cámara sino también que incluso puedan tener voz en la comisión correspondiente

incluso en la ponencia todavía no se han dado los pasos suficientes pero estamos en ello

garrido señores miembros de ayudas más justas ciudadanos que han firmado esta iniciativa trataré de explicarles por qué upyd va a votar

de esta iniciativa en primer lugar debo señalar que compartimos los argumentos del gobierno vasco expuestos en su criterio desfavorable no hay al parecer ningún miembro del partido nacionalista vasco que quiera explicar cuáles son los argumentos desfavorables del gobierno vasco yo porque en política además hay que dar la cara y hay que explicar a la ciudadanía por qué se vota sí o por qué se vota no y no hay que tener miedo a ningún tipo de debate y yo a pesar de que estoy solo y bastante rodeado en este parlamento creo que tengo la obligación

por qué voto que sí a determinada iniciativa o por qué voto que no en este caso a esta iniciativa son en todo caso mis argumentos que espero puedan ser respetados por el resto de grupos y en este caso concreto especialmente por el grupo popular

a este pleno ya digo que en primer lugar tengo que decir que comparto los argumentos del gobierno vasco expuestos en su criterio desfavorable uno la ley que se pretende modificar se aprobó por el parlamento vasco hace poco menos de siete años y no ha sido un periodo estable de implantación suficiente duradero en el tiempo

de las medidas adoptadas dos la ley afecta a las condiciones de vida de las personas más vulnerables y la mayoría de las propuestas recogidas en la ilp van en la línea de endurecer los criterios o requisitos de acceso a la misma fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena y tres todas aquellas modificaciones que se planteen deben ir en la línea de mejorar el sistema no de recortarlo nosotros compartimos estos argumentos expuestos

hay más argumentos para votar en contra de esta iniciativa por razones formales consideramos que la iniciativa puede ser considerada fraudulenta es una iniciativa impulsada por el pp vasco y en concreto por el exalcalde maroto

lo sabe y el propio pp lo ha dicho de hecho fue parte importante de su última campaña electoral es decir por decirlo claro

de una herramienta que trata de acercar la política a la ciudadanía cabe recordar además para explicar nuestro voto

cierto es que causa vergüenza recordar esa campaña pero hay que recordarla la campaña mediática impulsada por miembros del partido popular en euskadi para poner en cuestión el sistema vasco de protección social y especialmente la actitud absolutamente irresponsable e inaceptable del entonces alcalde de vitoria y parlamentario señor maroto que lejos de plantear un debate razonado sosegado y argumentado sobre medidas concretas para perfeccionar el sistema y reducir los niveles de fraudes existentes prefirió

del tipo que pueden llevar al enfrentamiento ciudadano y a la estigmatización de determinados colectivos a los que inicialmente señaló como responsables del fraude existente

que históricamente ha sido ejemplo de convivencia ciudadana pluralidad y mestizaje y protección social

más indignante no se eligió el debate político sosegado y argumentado sino voluntariamente la exageración e incluso la mentira

de manera irresponsable e injusta de esto sí que no hay demasiados precedentes en euskadi señora garrido de todo puede discutirse

más que una propuesta parlamentaria una pelea de barrio no todo vale para lograr supuestamente un puñado de votos y esta frase fue repetida por upyd en los diferentes debates en torno a esta cuestión el señor maroto realizó una serie de declaraciones absolutamente

señaló directamente a los magrebíes a los que acusó de no querer trabajar acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar y de vivir de las ayudas sociales y afirmó que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar como si todos los ciudadanos de un determinado lugar

los representantes del partido popular hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes que cobran las ayudas y del supuesto efecto llamada

algo que por cierto ni es cierto ni seria fraude en vez de promover estos prejuicios y realizar estas declaraciones todo representante político lo que debería hacer es impulsar la integración y la cohesión social si

podré continuar y explicar cuáles son mis argumentos que quiero exponer en este parlamento para explicar mi voto en contra y son todos estos y algunos más que diré después y si se me deja

digo que en vez de promover estos prejuicios y realizar estas declaraciones todo representante político lo que debería hacer es impulsar la integración y la cohesión social una cosa es denunciar el fraude existente y otra cosa es incendiar la convivencia una cosa es

y otra estigmatizar a determinados colectivos de inmigrantes una cosa es proponer mejoras para que el sistema funcione mejor y otra utilizar el racismo como instrumento político una cosa es defender las ideas en las que uno cree y otra alentar el miedo al diferente

denunciar comportamientos delictivos o el fraude y otra muy distinta optar por la generalización y el trazo grueso una cosa es utilizar datos concretos y otra inventárselos manipularlos o utilizarlos conveniencia como continuación de esa campaña surge esta iniciativa legislativa

los firmantes de esta ilp me dirán quizás que ellos no tienen culpa de los desvaríos de otros sin embargo el asunto es que esos desvaríos han envenenado el debate y ahí quería llegar yo los desvaríos previos impulsados por el señor maroto

el debate gracias a maroto no podemos debatir estas cuestiones en este parlamento no podemos debatirlas a fondo como consecuencia de que el pp ha envenenado voluntariamente ese debate y el debate efectivamente está

y el debate lo ha envenenado quien está detrás de esta iniciativa el pp ha envenenado voluntariamente este debate y por lo tanto

además evidentemente no compartimos el contenido de esta ilp efectivamente la mayoría de las propuestas que se plantean son básicamente recortes no compartimos por lo tanto el contenidode la ilp y pensamos además que no se dan las condiciones apropiadas abrir este melón precisamente el partido político que está detrás de está ilp es el que lo ha impedido con sus actuaciones y con su actitud seguro que la ley puede mejorarse y actualizarse pero esta es una vía equivocada y además está contaminada precisamente por los únicos que la apoyan y que además son los que están detrás de ella

ahora en euskadi es superar esta etapa maroto y que el rechazo de esta su iniciativa puede definitivamente cerrar por eso nuestro voto en contra la ley de garantía de ingresos

evidentemente puede mejorarse todos los grupos lo hemos dicho en esta cámara pero para eso hace falta consenso y juego limpio

los que tanto predican el diálogo hablar

a salir a esta tribuna o no hayan querido salir a esta tribuna simplemente

van a votar no a la toma en consideración de esta propuesta suscrita por miles de ciudadanos miles de ciudadano como decía de todas las ideologías

que estamos aquí sentadas y saben qué pasa que al final pues parece ser que eso les duele mucho porque lo saben

asunto es un asunto transversal como a ustedes les gusta decir es un asunto absolutamente transversal se trata de un asunto que preocupa a los ciudadanos porque han visto

han tenido la situación que han tenido muchos ciudadanos o que tienen muchos ciudadanos en la calle

las eficiencias de un sistema de protección los abusos que se dan en el sistema de protección todas esas cuestiones que ustedes acabaron reconociendo pero acabaron reconociendo como he dicho anteriormente ante la evidencia clara de los datos que

por encima y que además eran los datos oficiales de este gobierno por eso quiero decir que es muy triste

en un discurso dirigido a empresarios apele al diálogo al pacto

y ni siquiera apoyar el criterio desfavorable de este gobierno por lo tanto también mucha hipocresía política mucha desfachatez

que están muy lejos de estar en la democracia en la poca calidad democrática

a todos se nos llena la boca de participación este gobierno trae numerosos proyectos de ley con apartados que ocupan no sé cuantas hojas hablando de participación ciudadana y cuando luego se quiere hacer un ejercicio de participación ciudadana ustedes simplemente les ponen una mordaza y les dan una bofetada

tomarán nota de este gobierno y tomarán nota de los partidos políticos que hoy quieren silenciar su voz y mire señor maneiro tengo el gusto de debatir simplemente con usted y sí le voy a decir unas cuantas cosas mire no sé si no se ha enterado bueno y además ha hecho de defensor del gobierno luego el lehendakari se enfada mucho con usted y le dice esas cosas de que le repite cuatro veces las mismas cosas

repítale también el criterio desfavorable del gobierno que seguro que no le dice

las mismas cosas pero mire estamos en el debate de la toma en consideración de una propuesta de miles de ciudadanos no estamos hablando de declaraciones

de una iniciativa cuando siempre en esta cámara porque no hay precedentes se ha dejado de tomar en consideración una iniciativa similar

usted nos hablaba aquí de que va a reducir las firmas necesarias y se colocaba aquí

que quieren que participen en los debates de hoy que en

ni va a votar una propuesta de miles de ciudadanos y nos está hablando que quiere modificar la ley para que los requisitos sean menores y para que los ciudadanos que subscriben una iniciativa legislativa popular puedan hablar aquí en esta tribuna

eso es engañar a los ciudadanos señor maneiro eso es engañar a los ciudadanos y parece mentira que alguien engañe de esta forma a los ciudadanos alguien que además se erige en decir la verdad

pues miles de ciudadanos en vitoria han compartido muchas de las declaraciones del señor maroto y ahí están los resultados de las últimas elecciones

de su partido upyd en el ayuntamiento y en las juntas generales por cierto sí respetamos

es la voz de tantos ciudadanos que quieren acallar silenciar y a los que quieren dar una bofetada en toda regla como se va a ver aquí hoy en la votación no hay excusas señoría decía

usted está diciendo que las cuarenta mil firmas son ilegítimas señor maneiro

esa cuestión usted lo que ha quedado claro cuando ha salido hoy a hablar aquí es que se está burlando

y que ustedes usted también hoy aquí con su voto negativo aparte de dar un portazo está insultando a miles de ciudadanos y también me gustaría que aclarara una cuestión cuando saliera ahora aquí a esta tribuna está llamando racistas

que han traído aquí una propuesta simplemente para mejorar

y que nosotros como legítimos representantes de ellos tenemos el mínimo deber simplemente de escucharles señor maneiro

gracias presidenta me da la sensación señora garrido por su intervención de que usted no tiene ni idea de lo que es la democracia si alguien ha mostrado respeto

a los firmantes de esta iniciativa ha sido un servidor respeto absoluto a cada una de las firmas de esa iniciativa pero evidentemente respetar no puede significar darles la razón lo respeto por lo tanto los critico y llegado el caso

voto en contra de esta iniciativa porque no estoy de acuerdo esa es la democracia que ellos puedan defender libremente esta iniciativa y que el resto de grupos

que estamos en contra de esa iniciativa este es el asunto ese es el asunto sí

que ellos puedan defenderla y yo pueda criticarla ese es el asunto y ese es el juego de la democracia he llamado yo xenófobo racista
a alguno de los firmantes de esta iniciativa mesedez isiltasuna por favor silencio en absoluto en absoluto es algo que es absolutamente cierto y es que el señor maroto

varios meses realizó declaraciones xenófobas y racistas

incendió la convivencia y envenenó el debate relacionado con las ayudas sociales

que hay que escuchar a quienes os llevan la contraria que hay que escuchar

ahora estoy tratando de isiltasuna estoy tratando de plantear argumentos y digo que ellos tienen todo el derecho del mundo a presentar
esta ilp y yo tengo todo el derecho del mundo a bajar a la tribuna

en mi opinión no tienen razón y lo que es más importante y lo hemos repetido diferentes grupos durante los últimos meses han envenenado voluntariamente un debate una cosa es pretender plantear iniciativas para acabar con el fraude existente en las ayudas sociales algo que todos los grupos podemos compartir y otra cosa es utilizar ese asunto de manera irresponsable para atacar a las personas que en peor situación se encuentran en la sociedad en euskadi y eso es responsabilidad suya yo no he llamado xenófobo ni racista a ninguno de los firmantes he dicho que se planteó y se realizaron declaraciones racistas y xenófobas si no

ustedes que esta quizá sea la única ilp que no se vaya a tomar en consideración por qué ocurre esto por qué ocurre esto por qué

porque ustedes están detrás que fueron los que envenenaron el debate manera en este momento de hablar de este asunto de manera responsable y pausada porque ustedes incendiaron este debate e incendiaron la convivencia por qué el señor maroto no es alcalde hoy señores del partido popular por qué no es alcalde hoy por qué

en todo caso y en conclusión yo respeto perfectamente esta iniciativa me hubiera gustado que los firmantes hubieran

y evidentemente lo que yo no voy a hacer es dimitir de mis obligaciones como parlamentario que es

votamos en contra de la toma en consideración de esta ilp

pueden hacer lo que consideren o seguir incendiando la convivencia o en fin desde el consenso desde el diálogo

tratar de mejorar todas las leyes en vigor incluida también la ley de garantía

fruto de un amplio consenso que ha impedido abandonar a miles de personas en los peores momentos por ser un modelo eficaz que responde a nuestra idea de sociedad justa solidaria y cohesionada rechazamos cualquier fraude y también

de este sistema para estigmatizar colectivos como todo sistema registra fallos que se deben corregir como en todos los servicios públicos hay personas que hacen trampas y hurtan recursos públicos en beneficio personal

a este fraude sea en el servicio público sea en el sistema recaudatorio que sea quienes engañan deben ser sancionados como estipule la normativa defraudan engañan

no colectivos miles de personas han firmado una iniciativa para modificar la ley de dos mil ocho que regula la renta de garantía de ingresos

y les tenemos que decir que para eso no hace falta cambiar la ley porque esta ya prevé

en todo caso habrá que reforzar las vías que impidan ese fraude sean en lanbide

que es la que suelen elegir las personas que defraudan por tanto quienes han suscrito esta iniciativa

pero quien empujó hacerlo no les explicó que no había que cambiar la ley ha utilizado sus firmas y un discurso

electoral y finalizada la campaña hoy no está en este parlamento para defender su propuesta los y las socialistas rechazamos todo tipo de fraudes los que se dan en la renta de garantía de ingresos los que se dan en la fiscalidad mucho más cuantiosos para estos no ha habido iniciativa que cambie

que mi grupo ha impulsado también en esta cámara por eso

y rechazamos que esos fraudes se liguen a colectivos y porque quien promovió esta ley ni siquiera la defiende rechazamos se tramite una propuesta tramposa

este parlamento representa a los vascos y a las vascas trasladamos sus iniciativas a veces a través de los grupos parlamentarios a veces

esta legislatura hemos aprobado dos leyes la de fracking y la de la custodia compartida mostramos nuestras posiciones a favor o en contra con nuestros argumentos

firmado esta iniciativa merecen nuestro respeto y compartimos con ellas la preocupación la lucha contra el fraude pero que la vía elegida

como sabía perfectamente su promotor la renta de garantía de ingresos es un ejemplo en el ámbito estatal y se sitúa entre los estándares de protección

porque los que más progresan son no solo los que invierten en empleo en educación en sanidad en investigación los que más progresan son quienes toman todas las medidas para recuperar para la sociedad a las personas que más nos necesitan casi un año dedicábamos un monográfico a esta cuestión aprobábamos más de medio centenar de medidas que aún están por desarrollar algunas referidas a la lucha contra el fraude y casi todas orientadas a dar cobertura

ningún engaño ninguna persona excluida sin enfrentamiento entre quienes necesitan de la solidaridad del conjunto de la sociedad eskerrik asko

eta guretzat legebiltzarrean lege iruzurra egitea larria da eh bildu no tiene ninguna duda de que un grupo político ha cometido fraude de ley porque precisamente la ley que regula las iniciativas legislativas populares expresa claramente que la iniciativa legislativa popular se inspira

y este evidentemente no es el caso esta ilp no es el resultado de la espontaneidad social no es una iniciativa gestada en el pueblo sino que nació en el laboratorio de ideas de una sede política son los mismos que organizaron financiaron impulsaron

bertan todos los grupos tenemos derecho a proponer una modificación legal eh bildu está dispuesta a cambiar la ley lo que ocurre es que nuestros objetivos son

a los que hoy se plantean a lo que no hay derecho es a recurrir a la figura de la ilp con el único objetivo

aceptar a trámite esta iniciativa sería desvirtuar el sentido mismo de las ilp cuyo espíritu es la defensa y extensión de los derechos de las personas

recortar derechos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad además es una campaña de acoso y derribo contra los colectivos inmigrantes

no vamos a aceptar ningún tipo de recorte en derechos sociales ante una situación de crisis económica y social la solución nunca puede ser recortar derechos

esta iniciativa condena a miles de personas a vivir en la calle a pasar hambre y frío solo inmigrantes eh bildu nunca avalará esa barbaridad todas nuestras conciudadanas y conciudadanos todas las personas que vivimos aquí debemos tener garantizadas unas condiciones de vida dignas hayamos nacido en apatamonasterio

por otra parte se disfraza el contenido de la ilp para tratar de hacer ver que el objetivo es luchar contra el fraude de las ayudas sociales

prácticamente todos los cambios propuestos tienen carácter restrictivo el objetivo es que las personas inmigrantes tengan más difícil cuando no imposible recibir estos derechos es el mensaje de la extrema derecha eso de españa para los españoles que a algunos tanto les gusta por otra parte

es el colmo del cinismo no es aquí donde se decide que las pensiones sean tan miserables como son además les recuerdo que desde eh bildu se ha propuesto más de una vez en este parlamento deshacer los recortes en la rgi y la respuesta que se nos ha dado ha sido siempre que no

gaude y precisamente la iniciativa legislativa pretende todo lo contrario busca

rechazamos la estigmatización de uno de los colectivos más débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad y que más está sufriendo las consecuencias de la crisis por eso

el sistema de protección que tenemos es necesario permite una mayor cohesión social y evita en gran medida caer en la exclusión social a los y las perceptoras

el grupo nacionalistas vascos defiende el actual sistema de protección social que tenemos y trabajará por mejorarlo por hacerlo más viable sostenible y eficaz

a las personas que se encuentran en el eslabón más débil de nuestra sociedad

se muestra favorable a realizar un análisis sosegado sobre el sistema de protección social en su conjunto y ha anunciado públicamente la creación de un grupo de trabajo que estudia cómo mejorar y hacer más eficaz el sistema que tenemos este grupo continuará trabajando por la mejora del sistema para que las personas todas

puedan continuar percibiéndola para facilitarles una vida digna

de forma sosegada en la forma que entre todos establezcamos dejando a un lado intereses partidistas y buscando de verdad la mejora del sistema asimismo mostramos nuestro más firme compromiso por seguir trabajando en la mejora y refuerzo de los sistemas de control por la colaboración interinstitucional para erradicar posibles abusos y o fraudes y que se sancione y las infractoras conviene recordar la unidad de control de fraude creada en lanbide para perseguir los abusos y sancionar a los infractores y la colaboración también tanto de la ertzaintza como las policías locales

de algunos representantes políticos la denuncia constante sobre la existencia de fraude unida al origen de las personas perceptoras es irresponsable

las personas que necesitan de esta prestación para no caer en la exclusión social por lo tanto este grupo apoyará las iniciativas que supongan una mejora de los controles y rechazará los discursos iniciativas y propuestas que pretendan el endurecimiento de los requisitos de acceso por último decir a pesar de que han abandonado ya

legislativa popular merecen todo el respeto del grupo nacionalistas vascos estamos dispuestos a dialogar y a acordar dialogar para mejorar el sistema para optimizar los recursos para solucionar los problemas detectados pero no habrá diálogo si lo que persiguen

es dejar fuera de este sistema a uno de los colectivos más necesitados y como la base de la ilp pretende endurecer los requisitos de acceso para los y las perceptoras de rgi no ha obtenido el apoyo de nuestro grupo

detrás de esta iniciativa a nuestro juicio tanto del gobierno como del grupo que lo sustenta debemos mantener

el sistema de protección social que tenemos como herramienta imprescindible de fomento de la cohesión social

ibiltzerik el pnv el partido socialista y el partido popular cocinaron la renovación del tribunal vasco de cuentas públicas como lo vimos en junio pasado dejaron a eh bildu al margen del proceso seguramente porque eran conscientes

eso había sido la práctica habitual pero la voluntad firme de eh bildu es desterrarla para siempre por eso propusimos una proposición de ley

queremos garantizar la objetividad y la neutralidad política del tribunal vasco de cuentas públicas horretarako artikulu bakar batean

ez dago kontuen epaitegia txanpon giza erabiltzerik alderdien arteko negoziazioetan la elección de los miembros del tribunal vasco de cuentas deberá atender siempre a criterios de proporcionalidad según la representatividad de los grupos parlamentarios

lau herrialdeetan para garantizar la objetividad y la neutralidad política del tribunal es necesario hacer frente al riesgo de que haya políticos que se perpetúen en cargo públicos

no pueden ser agencias de recolocación de ex cargos públicos porque pierden toda su credibilidad jakin bagenekien

muy buenos días gracias señora presidenta comenzaré la intervención

haciendo mías las palabras de daniel innerarity es miembro de la comisión de ética del gobierno vasco en la revista auditoría pública de dos mil trece

las obscenas pasarelas entre política y control es uno de los grandes fallos de la democracia española creo que

una frase que dibuja claramente cuál es la situación y sobre todo enmarca muy bien el debate que hoy tenemos aquí considero señorías que este es un asunto importante y que va a servir en función del sentido del voto de cada uno de nosotros de cada uno de los grupos para ilustrar cómo nos posicionamos en el concepto del poder

el poder y qué tipo qué perfil de personas son las más adecuadas para administrar desde la independencia ese control que es necesario e indispensable para dotar a nuestras instituciones de la credibilidad perdida

no parece que al gobierno le parezca importante este asunto porque con sus actuaciones con sus hechos ha demostrado que no tiene ninguna sensibilidad al respecto

insisto importante no sé si lo más adecuado señorías a la hora de abordar este debate no sé si es más adecuado o es adecuado

sobre un nombre propio sobre josé luis bilbao pero sí tengo muy claro que este nombramiento les define les posiciona

en una clara concepción de que para ustedes es más importante tenerlo todo controlado en lugar de precisamente lo contrario controlar de forma externa a su gobierno no cabe ninguna duda de que al situar a un miembro de su partido

de cuentas y no uno cualquiera sino quien hasta hace unas horas porque fue cuestión de horas había sido diputado foral

en su despedida de decir que estuvieran tranquilos los que utilizaban dinero negro los que tenían cuentas en suiza los que defraudaban abiertamente porque él

que estas circunstancias define a un gobierno claramente en su arrogancia

y desprecio a nuestras instituciones de autogobierno este nombramiento tan descarado tan obsceno tan claramente contradictorio con la función de fiscalizar al gobierno digamos que ha sido la gota que ha colmado el vaso para proponer esta iniciativa de modificación de la ley de creación del tribunal de cuentas creemos que ha llegado el momento

que es por otro lado para lo que deberíamos estar aquí todos los presentes independientemente de nuestras diferencias ideológicas y reformar para qué

hasta que no transcurra un plazo prudencial de tiempo dos años como exigen otras regiones que también cuentan con estos órganos de control

hemos sido pioneros o vamos a ser pioneros y aquí por qué no señorías

profesionales independientes bien formados y con experiencia en sus respectivas profesiones de al menos diez años reformar también para que las recomendaciones del tribunal

no es la de reformar como lo han demostrado sino todo lo contrario tendremos que ser desde la oposición los que propongamos esta modificación

que plantea el partido popular tenemos que dejar de usar de una vez por todas a las instituciones y organismos y hasta clubes deportivos

esto no puede ser tenemos todos que retroceder y fortalecer a la sociedad civil y esta es una buena oportunidad para demostrar que la sociedad vasca y la política avanzan con madurez hacia nuevos tiempos donde la exigencia

no son una recomendación sino una obligación imperiosa de nosotros depende pero sobre todo de este gobierno también agilizar

instituciones que deben ser reconocidas y reconocibles en contextos nuevos y diferentes donde nombramientos

miembro de su partido nuevo presidente del tribunal de cuentas

en numerosos trabajos pendientes por ser incompatible con su cargo anterior no tiene un pase señorías no tiene un pase

e importante cargo del partido nacionalista vasco durante todos estos años y también señorías entendiendo que el voto va a ser positivo y que efectivamente esta reforma pasará el trámite

y que pasaremos también a trabajar sobre ello sí que quiero pedir que agilicemos entre todos el trabajo a esta cámara porque señorías

apruebe ahora mismo en la sesión de hoy iniciar los trabajos de modificación de una ley pero lo que luego nos encontramos la realidad es que pasa demasiado tiempo de que esas propuestas de modificación

me estoy refiriendo porque quiero recordar aquí también que

aprobada allá por el mes de febrero en junio es cuando sea por fin convocado porprimera vez se ha constituido esa ponencia

por eso señorías aquellos que tienen la responsabilidad

nacionalistas vascos que ese sí hoy a la modificación de la ley del tribunal de cuentas sea un sí también que sea ágil para que este parlamento también pueda como decía acompañar esa necesidad de credibilidad que tienen las instituciones y que nos están exigiendo los ciudadanos

sí gracias presidenta evidentemente vamos a votar a favor de la toma en consideración de estas proposiciones de ley porque estamos a favor de cambiar la ley del tribunal vasco de cuentas públicas de hecho el pasado mes de octubre ya presentamos una moción

que se pudiera constituir una ponencia que estudiara la modificación de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas con el objetivo de lograr su

y su profesionalización y lo cierto es que en aquella ocasión tanto el partido nacionalista vasco como el partido socialista de euskadi votaron en contra y por lo tanto se puede decir llegado este punto que hemos perdido un año si se hubiera votado a favor en marcha de aquella ponencia hace exactamente un año es posible que incluso a día de hoy ya tendríamos una ley nueva e incluso habríamos evitado la desvergüenza de que el señor bilbao sea hoy

tanto el grupo socialista como el grupo nacionalistas vascos hace un año

abrir ese debate y hoy sigue siendo una obviedad lo que llevamos años denunciando por otro lado

que el tribunal vasco de cuentas públicas está tomado está ocupado por los partidos políticos cada uno de los grupos políticos aquí presentes

y al mayor número de suyos posibles y su objetivo no ha sido ni es que el tribunal vasco de cuentas públicas funcione mejor y cumpla mejor sus funciones los suyos dentro del tribunal vasco de cuentas públicas defiendan mejor sus intereses partidarios esto es lo que ha venido ocurriendo en euskadi durante los últimos años y

hoy me temo que no tienen como objetivo mejorar el trabajo que realiza habitualmente el tribunal vasco de cuentas públicas sino la posibilidad de que los diferentes grupos políticos que han presentado estas iniciativas puedan colocar

de los suyos en ese tribunal vasco de cuentas públicas y eso es un hecho evidente en la proposición de ley planteada eh bildu lo cierto es que la negociación parlamentaria se ha centrado históricamente en general no tanto en el perfil técnico exigible al candidato sino en el número de miembros que corresponde proponer a cada grupo así la fidelidad

trayectoria en puestos de gestión política se convierte en elementos clave para la elección

de la iniciativa planteada por eh bildu eh bildu quiere incluir a más de los suyos en el tribunal vasco de cuentas públicas y por eso propone esta

que se abre la posibilidad de modificar la ley para efectivamente incluir medidas que vayan en la línea de la despolitización y la

bilbao en el tribunal vasco de cuentas públicas es una vergüenza absoluta y ya lo dijimos es posible que la elección del señor detrás de las iniciativas registradas tanto por el grupo popular como por el grupo eh bildu pero lo cierto es que nosotros ya en octubre habíamos planteado abrir este debate si recordamos aquellos hechos en fin

apoyó la elección del señor bilbao como miembro del tribunal vasco de cuentas públicas y que el partido popular y eh bildu lo criticaron pero igualmente

esto es un hecho todos los grupos políticos aquí presentes salvo upyd trataron de colocar a los suyos en el tribunal vasco de cuentas públicas

ese tribunal vasco de cuentas públicas el objetivo no era que funcionara mejor sino que una vez dentro de ese tribunal vasco de cuentas públicas defendieran mejor los intereses de cada uno de ustedes y de sus grupos políticos del partido nacionalista vasco del partido popular del grupo socialista y de eh bildu todos

de colocar a los suyos los grupos alzan la voz cuando se sienten perjudicados en la cuota que le toca nosotros sin embargo seguimos pensando que hay que cambiar

observemos qué es lo que ocurre en navarra por ejemplo podemos ir más lejos ver qué

ver por ejemplo y estudiar el modelo anglosajón como posiblemente

para garantizar esa profesionalización del tribunal vasco

lo contamina todo que sus miembros sean elegidos por los grupos parlamentarios lo mismo y es algo además vergonzoso y evidentemente que el señor bilbao salte

a la presidencia del tribunal algo que clama al cielo y ahora por lo tanto se trata de impulsar las reformas legales pertinentes para devolverle

al tribunal introducir los cambios que se consideren necesarios y modernizarlo profesionalizarlo y despolitizarlo en relación a las iniciativas que se plantean en la justificación de la iniciativa de eh bildu se habla de garantizar la objetividad y la neutralidad política

indispensable para que pueda cumplir correctamente su función dice que esta ley establece la obligación de que el parlamento designe a los miembros de ese organismo de forma proporcional

de los grupos parlamentarios y dice que la objetividad y la neutralidad política del tribunal se ven cuestionados y personas que han desempeñado responsabilidades políticas

y directamente pasan a formar parte de dicho tribunal es decir eh bildu plantea básicamente dos quejas que eh bildu no haya podido nombrar a más miembros suyos del tribunal vasco de cuentas públicas y que el partido nacionalista vasco efectivamente haya podido enchufar al señor bilbao pero

ellos también quieren colocar a su gente dentro del tribunal vasco de cuentas públicas

y esto es en nuestra opinión lo que hay que cambiar no solamente el perfil técnico de los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas sino cambiar el sistema de elección y hay modelos muy interesantes fuera de nuestro país que van en esa línea el grupo popular habla de que efectivamente los órganos de control y fiscalización de la actividad política e institucional deben garantizar en su ejercicio o funcionamiento y composición

objetiva que despeje cualquier sombra de sospecha sobre posibles vínculos partidistas o control de los partidos políticos y a partir de ahí plantea una serie de medidas que siendo en general todas ellas positivas lo cierto es que

son insuficientes porque se mantiene el sistema será este parlamento quienes elijan a los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas y por lo tanto las medidas que plantean unos y otros

la despolitización y la profesionalización del tribunal de cuentas públicas nosotros en todo caso votamos a favor de la toma en consideración y plantearemos nuestras enmiendas correspondientes es curioso que el grupo popular meta en su exposición de motivos conceptos como independencia e imparcialidad ya digo porque el grupo popular también

y también al señor representante de eh bildu si están de acuerdo con ello

y el grupo eh bildu y evidentemente el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista

dentro del tribunal vasco de cuentas públicas o si van a proponer el cambio de modelo que es lo que nosotros vamos a proponer hablaba usted señora quiroga de la politización de determinadas instituciones y de impulsar determinadas medidas para regenerar la vida política y profesionalizar determinados organismos van a impulsar ustedes alguna medida para despolitizar la justicia

en el consejo general del poder judicial van a seguir colocando

en el tribunal supremo van a seguir colocando en los diferentes órganos estatales reguladores porque hasta ahora es lo que han hecho

todos esos órganos el partido popular junto con el partido socialista reiteradamente en contra por lo tanto a favor de la toma en consideración a pesar de que se incluyen medidas que son claramente insuficientes hay que incluir medidas que vayan en la línea de despolitizar y profesionalizar el tribunal vasco de cuentas públicas y hay que cambiar

para que los partidos políticos dejen de colonizar a las diferentes instituciones y en concreto al tribunal vasco de cuentas públicas tal como está